y el derecho legítimo de las personas trabajadoras a reivindicar mejoras en las condiciones laborales solo cabría el debate de la adecuación y la proporcionalidad de las acciones

de objetivos lícitos los sindicatos defienden los intereses de sus trabajadores

y el gobierno los intereses públicos de la ciudadanía en general ambos son legítimos

pero la exigencia al gobierno es que defienda los intereses generales y que gestione con racionalidad y eficiencia los servicios públicos en este caso los de la seguridad ciudadana

con acusaciones graves contra usted y su departamento así como al propio lehendakari acusaciones de ausencia absoluta de voluntad de negociación por su parte la escalada está llegando a la persecución continua tanto al lehendakari como a usted misma

y hasta la utilización de informaciones personales que si resultan graves en cualquier funcionario público

la búsqueda de objetivos legítimos como son la mejora de las condiciones laborales no puede justificar cualquier tipo de actuación y en este momento creo sinceramente que estamos bordeando los límites es cierto que los funcionarios están siendo afectados en sus condiciones laborales

en la mayoría de los casos por imposición del recurso a la normativa básica por parte del gobierno español pero no es menos cierto que esos sacrificios no son privativos de los empleados públicos y es más en la mayoría de los casos están resultando mucho menos dolorosos que los de la mayoría de trabajadores del sector privado

sino absolutas se cuestionan todas las políticas públicas de seguridad en lo que parece un exceso que no está soportado en los datos sobre delitos seguridad

sino más bien en una estrategia de presión al departamento un exceso que no se corresponde con la percepción general que la sociedad tiene

sobre la atención y los servicios de seguridad que reciben los ciudadanos desde las comisarías ante esta situación señora consejera le planteo la siguiente pregunta qué iniciativas negociadoras ha tenido el departamento con los sindicatos de la ertzaintza
a lo largo del año dos mil catorce eskerrik asko eskerrik asko

y los sindicatos tienen representación en el consejo de la ertzaintza

llamada mesa ciento tres son órganos que están regulados por la ley de policía en dos mil catorce entre el consejo y la mesa se convocaron doce reuniones doce reuniones a las que

y en esas tres ocasiones no pasaron del punto uno del orden del día en lo que va de año hemos convocado tres reuniones más y la respuesta ha sido ausencia absoluta de los sindicatos no se sientan no proponen en las mesas de negociación y protestan en la calle y ese ha sido el escenario y la dinámica de todo un año de acción sindical pancartas y concentraciones de delegados sindicales en actos públicos y también en lugares institucionales y una manifestación el martes pasado en bilbao convocada con tres meses de antelación

y lo hace dentro de la normalidad del servicio que ofrece cada día un servicio bien valorado por la ciudadanía

las nuevas estructuras y se van tomando medidas para ir afianzando el modelo policial que queremos hoy y que queremos en el futuro y en este modelo la

anular no puede sustituir la responsabilidad sindical de proponer

acordar por eso desde mi responsabilidad seguiremos convocando los órganos de interlocución y de negociación cada vez que sea necesario borondate

son muchas las medidas organizativas que hemos tomado a lo largo de este tiempo

cada ertzaina tenga una plaza en propiedad limitando al máximo el número de comisiones de servicio

a la hora de acordarlo la posibilidad de cobrar tres de los cinco días por asuntos propios y disfrutar los otros dos hemos cumplido todos y cada uno de los compromisos

estamos pagando todas las compensaciones por desplazamientos vestuarios dietas todas aquellas que regula el decreto

a partir de los cincuenta y seis años pero yo tampoco quiero ocultar una realidad

y las empleadas públicas la congelación salarial de estos años la ertzaintza no es una isla y mucho menos una isla abandonada lamento que los delegados sindicales

en desacuerdo permanente porque no es la realidad porque no es la imagen real del trabajo que todos y cada uno de los días

en cada una de las unidades en el día a día la ertzaintza es un ejercicio permanente de servicio público

es la misma responsabilidad que cabe exigirles a los sindicatos la responsabilidad de volver a la vía de la negociación a la vía del diálogo a la vía del debate y a la vía del acuerdo insisto en esto

que esto siguiera de esta manera por ello vamos a poner todo de nuestra parte espero la misma responsabilidad por parte

lokomotoretako bat ferrocarriles de la generalitat de cataluña enpresari alokatu zitzaion esan bezala hilean

egun on denoi bien consejera dieciocho de febrero carnavales de tolosa tres agentes agredidos cuando acuden a identificar a varias personas que estaban participando

coinciden en la inexistencia de un operativo especial la carencia del material necesario y la falta de apoyo del departamento veintiseis de febrero vitoria

lanzan cuarenta kilos de piedras a los agentes y el dispositivo consistía en una furgoneta con media docena de agentes y al comenzar los incidentes

refuerzos pero los antidisturbios llegan tarde la explicación oficial es que en bilbao había esa tarde un partido de alto riesgo tres de marzo vitoria un grupo de encapuchados queman contenedores y arrojan objetos contra los agentes de la ertzaintza que garantizan la seguridad

que estaban manifestándose esa tarde por el centro de la ciudad la comisaría de vitoria se había reforzado ante la posibilidad de altercados que son habituales en esas fechas

consejera falta de seguridad en el desarrollo de su trabajo nosotros para que quede claro lo tenemos claro sabemos que los responsables de los incidentes son los violentos ellos son los que causan daños personales y materiales pero el responsable de la seguridad

es consejera el gobierno vasco se lo recuerdan entre otras cosas y entre otros sitios

es que esa actitud le ofende que le ofende esa forma de protestar por eso nosotros vamos a utilizar la fórmula parlamentaria y le preguntamos qué medidas va a tomar la consejería para defender a los ertzainas y evitar o minimizar en lo posible

egun on berriro ere señora gallastegui hablando de medidas de seguridad tengo que recordarle cosas evidentes tan evidentes como que

reciben una formación inicial importante sobre procedimientos policiales y también sobre autoprotección nueve meses en la academia y otros tantos de prácticas en unidades policiales a esa formación inicial después a lo largo de su carrera se va incorporando y ampliando con cursos de actualización con cursos de

pero son muy importantes también los análisis previos que se hacen antes de cada una de las actuaciones y también los análisis posteriores después de cada una de las actuaciones análisis que abarcan también como elementos prioritarios la seguridad de los propios agentes

a las necesidades de cada situación y esa es la forma habitual de trabajar de los profesionales que planifican y ejecutan las intervenciones tanto las intervenciones asistenciales como las de seguridad cientos de intervenciones al día por cierto y usted sabe que por mucho que sencillas que parezcan las

no están exentas de un cierto riesgo muchas veces incluso a veces como digo difíciles de prever por todo ello es nuestro deber

seguir trabajando en el análisis en la planificación y en la evaluación para garantizar salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y también la de los agentes

en la segunda ocasión pero yo sé que es duro porque a veces es muy duro pero también suele ser muy positivo hay que reconocer de vez en cuando que si todo el mundo vienen en dirección contraria a lo mejor el que se ha equivocado ha sido el que se ha cambiado de sentido y no todos los demás

ver que cuando todos los grupos coincidimos en una determinada posición a lo mejor el que se equivoca es el gobierno

sindicatos y agentes de uno en uno comparten una misma visión y una misma posición en este país de tan difíciles unanimidades de tan difíciles unanimidades a lo mejor quien más

que protesta porque no le hace caso y porque no le quieren escuchar

este servicio público el que debe garantizar la seguridad la seguridad de todos nosotros

su idea de seguridad no se corresponde con las necesidades de seguridad que tienen los ciudadanos sus planes especialmente el plan horizonte dos mil dieciséis son la mejor

entre lo que ustedes imaginan que debe ser y lo que de verdad ocurre en las calles como en otros servicios públicos consejera porque en realidad se lo estamos repitiendo todos los días ustedes tienen un serio problema con todo aquello que es servicio público

esos servicios a la gente les pasa con los sanitarios les pasa con los trabajadores de radio euskadi

empleados públicos con esa ley que han planteado y también con los agentes de la ertzaintza pero su gobierno sigue culpando a los demás y su plan horizonte

ni aprecio por los detalles ni siquiera sentido común en la forma de organizar el trabajo policial ustedes nos anuncian una serie de reuniones negociadoras y le estamos augurando consejera el mismo resultado un futuro similar al de otras propuestas públicas
y todo por entender por no hacer un ejercicio de intentar entender eskerrik asko gallastegui andrea beltran de heredia andrea zurea da hitza

objeto de la pregunta porque a veces recurrimos recurren a argumentos simplistas muy simplistas sobre todo a la hora de referirnos a actuaciones de la

y cito por ejemplo los incidentes que usted ha citado los incidentes de tolosa si falta planificación mas planificación si faltan recursos más recursos si faltan medios más medios

sindicales de la retorica sindical y a partir de ahí nos olvidamos de los hechos y nos olvidamos de los malhechores por centrarnos en el caso de tolosa que usted ha mencionado porque creo que es un ejemplo claro primero

las planificaciones todas las intervenciones se planifican previamente por la ertzaintza

y entre todos los incidentes que tuvieron que atender efectivamente hubo este el que nos ocupa hoy el que ha servido de referencia que

una pelea una pelea a la que también acudieron agentes sin

una persona ajena a la pelea es la que agredió al reconocer a uno de los agentes no uniformados y se inicio allí la pelea la agresión a los agentes

ese minuto se convirtió en un minuto de gloria mediática para aquellos agresores que además tuvieron la desfachatez de dar una rueda de prensa también inculpando o denunciando supuesto acosos a la ertzaintza una vez más la prueba del algodón para la ertzaintza

insisto no tengo reparos en reconocer que a veces también desde dentro también desde dentro desde el entramado de las protestas sindicales contribuyen a poner el foco mediático

se olvidan de matices muy importantes matices como que en la ertzaintza el funcionamiento habitual dispone de vías de control

gracias señora presidenta muy buenos días buenos días lehendakari

para ustedes lehendakari esta noria sobre lo que somos o dejamos de ser los vascos es un motor que les sirve

todo el día dando vueltas sobre lo que somos un día lo importante es el derecho a decidir otro día lo importante es un nuevo encaje para euskadi a principios de este año eh bildu presentó la vía vasca su propuesta de proceso constituyente para la creación del estado vasco apenas dos días después

con la propuesta de un nuevo pacto nacional entre vascos que nos permita dar un salto en nuestro estatus político y en la recuperación de la soberanía originaria de nuestro pueblo

cuando ya se han venido arriba el señor erkoreka sale rápidamente como portavoz del gobierno y dice pero todo esto

que se está desarrollando en el parlamento cada poco tiempo esa pugna entre nacionalistas se repite y el último episodio es un acto de su partido en la que una dirigente del mismo dice que la nación vasca se construye con hechos y no con palabras

a qué hechos se refiere su compañera de partido qué es eso de la nación vasca y si cree que ese concepto de nación para euskadi es el mas apropiado

sailburuok jaun andreok egun on guztioi señora quiroga a qué hechos se refiere mi compañera de partido

a mi me pregunta con qué hechos pretende el lehendakari materializar la construcción de la nación vasca

lo que dijo mi compañera de partido la presidenta de la ejecutiva territorial del partido nacionalista vasco en bizkaia fue

y es una declaración que comparto plenamente y se lo digo obras son amores y no buenas razones y también le digo que las palabras deben ir acompañadas de los hechos

y para mí los hechos constructivos pasan primero por la defensa del autogobierno para comunidad autónoma del país vasco de euskadi

pasan por su actualización y pasan por su avance en el nuevo contexto europeo y defiendo la exigencia del cumplimiento íntegro del estatuto en su espíritu y en su letra defiendo la singularidad

y la piedra angular del concierto económico defiendo la regularización jurídica del concierto llamado blindaje del concierto económico que ustedes votaron en contra defiendo los trece recursos presentados ante el tribunal constitucional ante los intentos de la amenación del estatuto vasco por parte del gobierno español defiendo la culminación del estatuto

debería estar comprometida y que podría pasar y podría empezar por facilitar la transferencia como por ejemplo la gestión de autopistas en régimen de concesión las líneas de ferrocarril en euskadi el fondo de garantía salarial materias ya avanzadas ya apalabradas con el gobierno español y que el partido popular se niega

para mí la construcción nacional son hechos y la construcción nacional empieza por la defensa del autogobierno contemplado en el estatuto y evitar la laminación de este hecho

de construcción de la nación vasca como digo usted se presentó como defensora del estatuto vasco ante el gobierno español pues aquí tiene también la oportunidad de pasar

gracias señora presidente mire lehendakari si lo que usted ha dicho hoy aquí

con ese marco jurídico que ahora mismo nos da ese encaje en españa

yo estoy de acuerdo con usted lo que no entiendo es porque su partido una y otra vez se ve en la necesidadde tener que decir otras cosas porque llegados a este momento yo le tengo que preguntar usted está de acuerdo con lo que propone su partido porque su partido lo que está proponiendo es partir desde el autogobierno

y yo lo que creo que usted tiene que decir con claridad en este parlamento es qué quiere para euskadi cuál es el futuro que propone para euskadi qué significa el nuevo status porque yo le he leídosu propuesta

porque eh bildu hacía una propuesta de nueva nación vasca con qué nos quedamos lehendakari usted es consciente de las consecuencias que tiene el hecho de que su partido

a la ambigüedad en algo tan importante como es nuestro marco jurídico usted es consciente de las consecuencias económicas que puede tener eso para nuevas inversiones usted se da cuenta de que estamos en un momento en que en el siglo veintiuno cuando todas las naciones están cediendo competencias hacia una propuesta como la que ustedes parece ser que hacen solo los fines de semana y cuando estamos en campaña electoral

sería ir contra lo que está marcando ahora mismo el mundo

para sumar para ser más grandes para tener

lehendakari yo le pido claridad en este parlamento le pido claridad con los vascos nosotros sí como partido popular claro que estamos comprometidos con el autogobierno con las competencias que tiene euskadi con la capacidad que tiene euskadi no para confrontar y enfrentarnos continuamente con españa y buscar

nosotros hablamos de colaboración nosotros hablamos de esa cohesión entre todos desde nuestra singularidad claro que sí pero creo lehendakari

y según lo que ha dicho aquí no nos haga perder tanto tiempo con esos nuevos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea resulta que si

por qué su incumplimiento por parte del gobierno español por qué su incumplimiento señora quiroga mire este parlamento ha aprobado hechos que refuerzan el autogobierno vasco y lo ha hecho

el problema es que el compromiso del gobierno español con euskadi es cero el gobierno español ha preferido la unilateralidad ante las propuestas de avance en el autogobierno y el hecho

el hecho cierto es la recentralización y la imposición el hecho cierto son los trece recursos ante el tribunal constitucional porque no hay interlocución ni voluntad política de acuerdo el hecho cierto es que las promesas que el gobierno español airea a bombo y platillo son palabras vacías el hecho cierto es que no apuestan por el aeropuerto de foronda

o por jundiz no apuestan por el soterramiento de la red ferroviaria o por la conexión del tren de alta velocidad

y cero hechos al desarrollo cero hechos mire repito que la defensa del autogobierno contenida en el estatuto y su actualización y avance

para mi construir nación es trabajar día a día por materializar el cumplimiento

un nuevo tiempo político en euskadi pero que no empezamos de cero me llama la atención que usted abrace un proyecto que en el mes de marzo del año dos mil quince del siglo veintiuno en el que estamos venga a decirnos

o en todo caso que habría de empezarse por un papel en blanco a estas alturas un papel en blanco mire la vía vasca que ustedes proponen es un papel en blanco usted y su partido eusko alkartasuna

en el libro del autogobierno vasco y no entiendo que pueda aceptar un papel en blanco no lo entiende nadie que conozca y reconozca el camino de euskadi en el autogobierno

y autogobierno buruaren jabe izatea autogobierno

y esta vocación se ha escrito se ha institucionalizado política y jurídicamente a través de sus derechos históricos

recoge de forma expresa que el pueblo vasco no renuncia a sus derechos históricos

la historia de euskadi está escrita no está en blanco señor urizar el desarrollo de la comunidad autónoma de euskadi constituye un claro ejemplo del recorrido realizado

y es cierto y yo lo denuncio cuantas veces es necesario

y disfunciones están descritos y están escritos por este mismo parlamento del que formamos parte quienes aquí estamos presentes y es cierto también que la actualización del autogobierno es un asignatura pendiente

de este país ahora bien no estamos en blanco esta es una asignatura muy trabajada muy trabajada aquí y también como usted dice en otras comunidades políticas en europa cada una desde su realidad a nadie se le ocurre decir que el futuro de nuestro autogobierno se escribe sobre un papel en blanco pregunte usted en escocia o en cataluña o en flandes si sus aspiraciones las han manifestado

o las han manifestado tras partir de una realidad contrastada y le hablarán de la nueva realidad de europa atendiendo siempre a los principios fundacionales

al respeto a la pluralidad al concepto de integración se integra lo que existe y el autogobierno vasco existe no está en blanco y usted lo conoce tan bien como yo como usted lo conoce bien le diré que no llego a entender que usted y eusko alkartasuna abracen

declarado de insubordinar las instituciones usted ahora se suma a una cadena de rupturas multinivel para avanzar en un proceso que para mí es

actos de desobediencia e insubordinación a los marcos institucionales lo han dicho ustedes

nos vamos incluidos los propios ámbitos institucionales incluido por lo tanto este mismo parlamento o el gobierno vasco yo no comprendo que usted ni su partido eusko alkartasuna se embarque en un camino que reconoce

lo dicen ustedes esta señor urizar no es la vía vasca esta es insisto la vía revolucionaria

de inestabilidad política y social y económica para este país a pesar de que usted reivindique burujabetza ekonomikoa eta soziala

este parlamento aprobó esta propuesta por mayoría absoluta no estamos en el papel en blanco tampoco en la espera de brazos cruzados ni en la reivindicación permanente

la del grupo nacionalistas vascos y la del partido nacionalista vasco ha sido siempre volver a intentarlo la construcción de la nación vasca en el día a día ahora tenemos que reintentarlo en un nuevo escenario en un nuevo escenario

sin violencia y con la participación de las cuatro tradiciones políticas vascas ahora tenemos que reintentar un acuerdo interno que fortalezca nuestro

en este nuevo tiempo tenemos la oportunidad de superar el contencioso vasco con un acuerdo genuino y de integración entre las diferentes sensibilidades ideológicas que nos permita alcanzar un nuevo pacto posterior con el estado aro berria bizi dugu bai eta itun politiko berri bat adosteko aukera dugu bai

eta aitortu egin behar da señor urizar la ponencia de autogobierno ha nacido

con el reto de realizar un diagnóstico constructivo y compartido del desarrollo del autogobierno vasco hasta ahora pero también creo que mirando al futuro

ese es mi deseo con la aspiración de poder propiciar el máximo consenso político posible y un consenso que usted apela o al que apela sustentado en el diálogo y lo único que no está escrito es el resultado de esta ponencia efectivamente

entiendo yo que a propuestas y textos concretos y nuestro objetivo político aboga por la necesidad

acuerdo que usted mismo reivindica incluyente entre las diferentes sensibilidades políticas del país un acuerdo compartido tramitado en las instituciones competentes

y que sea respetado y este acuerdo necesita de la participación si es posible de todas y de todos participar significa sentarse presentar las propias propuestas asumir que nos todos pensamos lo mismo aceptar que negociar es ceder y que ceder es necesariopara poder alcanzar acuerdos

levantarse de la silla rasgarse las vestiduras y decir que nada es posible lo fácil es pretender empezar de cero cada vez

que nos vamos y quedarnos lo fácil es decir que nos insubordinamos pero nos mantenemos en las instituciones

llegar a acuerdos con el gobierno español y tener una representación en las cortes generales del estado español para qué lo que este país necesita

un nuevo pacto político que recoja la libre voluntad de la sociedad vasca

un pacto un acuerdo en el seno de la sociedad vasca un acuerdo basado en un nuevo proyecto de futuro para la euskadi global que contemple las claves de un autogobierno legitimado socialmente

en un acuerdo interno que nos fortalezca para plantear un nuevo pacto con el estado un pacto con el estado este es un procedimiento que conecta con nuestra tradición foral

nuestras dos experiencias estatutarias la historia del autogobierno vasco está escrita nuestro autogobierno contiene una reserva expresa de los derechos históricos

en una visión de futuro es el desarrollo de nuestro autogobierno se trata de reivindicar nuestro desarrollo orgánico como nación está escrito y supondría actualizar

validar el derecho a poder ser consultados sobre nuestra verdadera vertebración política respetando los procedimientos democráticos establecidos

gracias señora presidenta muy buenos días de nuevo presentaba esta interpelación al lehendakari creo que me va a contestar el señor consejero una

en relación con un anuncio que ha hecho este gobierno en una materia que a nosotros nos parece importante como les digo un anuncio por el cual el gobierno va a modificar el decreto

unas ayudas que están recogidas en la ley trece barra dos mil ocho de apoyo a las familias yo quisiera colocar en su contexto

la aprobación de esta ley de apoyo a la familia porque me tocó debatir

ha sido una ley trabajada que al menos en el caso del partido popular su apoyo a esta ley no fue fruto de la

sino porque creíamos que incidía en uno de los problemas más importantes que tiene el país vasco euskadi

con unas estimaciones que dicen que en los próximos años hay algunos estudios que lo colocan en los próximos diez años

del país vasco envejecerá hasta unos términos que colocan en que un veinticinco por ciento de la población vasca será mayor de sesenta y cinco años hoy ya señor consejero el número de personas mayores de sesenta y cinco años es mayor que el número de menores de veinte años

de los últimos años nos indican un descenso paulatino como le digo esa ley en ese momento tenía un objetivo claro

en uno de los problemas estructurales que tiene el país vasco que es su envejecimiento su paulatino envejecimiento con las consecuencias que esto trae para el futuro de nuestra tierra fundamentalmente el que nos convirtamos en una sociedad de jubilados en una sociedad que cada vez tiene menos gente activa trabajando y por tanto creando los recursos necesarios para mantener la calidad de vida de la que creo que nos sentimos orgullosos todos los vascos y que estamos

a conservar en nuestra sociedad bien como le digo esta ley establecía una serie de ayudas que iban dirigidas

a ese intentar que aquellas parejas que desearan tener varios hijos pudieran hacerlo y que el tema económico no fuera al menos en principio

uno de los condicionantes que les llevara a tomar o limitar esa decisión en este sentido se aprobaron unas ayudas

nacimiento de hijo unas ayudas que en aquel momento fueron revolucionarias

se aprobó en la época de zapatero esto era una ayuda continuada durante

con niños con discapacidad también eran generosas creo que en ese sentido fueron unas ayudas que realmente

en este sentido también se articulaban una serie de medidas que ayudaran a la conciliación de la vida familiar y laboral

que no van a contar con los recursos suficientes porque creo que

una estrategia clara por parte de este gobierno de desincentivar aquellas mujeres que quieran solicitar esta ayuda porque saben que ese año no la van a recibir y que ya veremos si la reciben el año siguiente como le digo en esa misma

recursos suficientes para las ayudas a la conciliación también nos anuncian que van a cambiar los criterios en cuanto a la adjudicación de las ayudas por hijo

supone un retroceso porque no sé qué números habrán hecho ustedes pero eso es un retroceso es un retroceso que además va en contra del espíritu de la ley de apoyo a la familia

en los principios que inspiran esta ley aparece el de la universalidad y no es casual que aparezca este principio si aparece este principio

de esta ley además de incidir en uno de los problemas que tenemos estructurales en el país vasco era hacerlo de la mano de europa

formamos parte de europa y que tenemos que ir en la misma dirección y que euskadi seguía la senda marcada por europa con esos objetivos dos mil veinte

y que se están aplicando en el resto de países y que desde luego no van en la dirección que nos está planteando el gobierno vasco que es de retroceso sino de ir cada ve siendo más amplia

de los países el argumento que se nos ha dado una y otra vez por parte del gobierno no solo del gobierno sino cuando también en este parlamento el grupo parlamentario que

de estas manifestaciones el argumento que se nos da es que se ha abierto un proceso de reflexión

entienden que estas ayudas no ha tenido el efecto que se deseaba o que se buscaba y que por tanto hablen de un proceso de reflexión permítame que aquí le diga es raro esta forma de actuar que tiene el gobierno porque

pero aquí ustedes toman las medidas y luego nos dicen que están inmersos en un proceso de reflexión creo que este es el momento para conocer exactamente cuáles son los motivos

estas medidas cuáles son los números cuáles son los datos

este gobierno porque ahora lo que estamos viendo son recortes ahora lo que estamos viendo es una inmediatez que necesitan ustedes recortar que necesitan ajustar el presupuesto

fácil una parte que además no les está suponiendo en principio por lo que ustedes han debido de calcular una excesiva movilización social pero que muy al contrario va a tener una incidencia

de esta tierra en la sociedad que vamos a tener en un futuro próximo estamos hablando de algunos estudios que fijan

por eso yo le quiero preguntar señor consejero qué reflexiones están haciendo esos recortes son fruto de qué reflexiones en política

son reflexiones basadas en números en qué políticas cuáles son sus referentes a la hora de tomar estas decisiones porque creo que nos merecemos una explicación más allá de esa cantinela que una vez

por parte del gobierno de que están inmersos en una reflexión y que esa reflexión les hace tomar
esas decisiones muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko

usted hace referencia a la ley trece barra dos mil ocho de apoyo a las familias y sin embargo su discurso se enmarca en un contexto más amplio

y con los bajos índices de natalidad que tenemos cosa que no podemos discutir nadie y creo que tenemos que distinguir los dos planos una ley concreta una política familiar de natalidad integral que deberemos desarrollar

de reflexión estratégica y en la que espero además que podamos coincidir pero el decreto al que me tengo que referir en este momento

el martes no suprime el carácter universal de las ayudas señora quiroga no lo suprime nadie va a perder el derecho a percibir una ayuda por hijo o hija

como un derecho subjetivo no sujeto a disponibilidad presupuestaria que alcanza a toda la ciudadanía de euskadi

nosotros no venimos a cambiar la ley simplemente estamos desarrollando una previsión de esa ley hay que distinguir con claridad dos conceptos

y las ayudas a la conciliación por otro lado y por otro lado las políticas de promoción de natalidad como se lo he dicho antes las primeras las ayudas no son más que una parte de las segundas es más una parte yo diría discreta

ayudan pero no son cruciales en su decisión de tener más hijos e hijas no han sido cruciales en la decisión de usted ni mía en la decisión de tener los hijos que hemos tenido

culturales y económicos que afectan con diferentes matices a todos los países de nuestro entorno y es verdad que a nosotros más las políticas destinadas al apoyo a la natalidad abarcan prácticamente no solo toda la acción de nuestro gobierno vasco sino también el resto de instituciones también de los agentes sociales que influyen en las condiciones y modos de vida

especialmente económicos laborales y culturales todo aquello que tenga incidencia sobre la promoción del empleo de calidad

todo aquello que se refiere a la igualdad de acceso a las mujeres a todos los ámbitos de la actividad incumbe a las

el sistema educativo la prestación sanitaria la existencia o no de guarderías los horarios laborales que facilitan la conciliación y eso no es siempre

las ayudas a la conciliación el transporte público los entornos sociales los entornos urbanos todo tiene incidencia en la decisión de nuestras parejas de tener

nosotros podemos hacer lo suficiente para esto

de empleo y políticas sociales estamos inmersos en ese proceso de reflexión al que usted ha hecho referencia

que lo estamos haciendo con serenidad y con profundidad sobre cuál es la estrategia más adecuada para euskadi en esta materia

y eso no ha impedido que paralelamente y ahora me centro más en la ley hayamos hecho una revisión de las salidas vigentes en la ley trece barra dos mil ocho

de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo como en la modificación del decreto de ayudas a la conciliación familiar y laboral estamos tratando de dar respuesta precisamente a la previsión del artículo seis de la propia ley no estamos inventando

la ley actual prevé la necesidad de establecer sistemas de estandarización lo dice la ley de la renta familiar que permitan dar un trato más equitativo a los distintos tipos y situaciones familiares y que serán aplicables a las ayudas económicas

bien como condición de acceso bien como criterio para la determinación de la cuantía

estos sistemas de estandarización de las rentas familiares consisten y entro un poco al detalle

que tratan de ponderar la renta la renta clásica que nosotros entendemos como la base imponible de nuestros impuestos

en función no solo del número de miembros de la unidad familiar sino introduciendo también la composición de esta unidad partiendo de considerar que un mismo nivel de ingresos

en términos de poder adquisitivo a unidades familiares que tienen diferentes composiciones cómo hemos abordado este proceso

aumentando sus ayudas y reduciendo las ayudas a las rentas más altas por qué hemos hecho esto

por lo menos ayudamos a combatir una cuestión fundamental de nuestro sistema que es la pobreza infantil hemos contemplado el efecto conjunto de las ayudas a la conciliación y a las ayudas por hijos e hijas de manera

sea neutro a efectos presupuestarios para el departamento yo sé que eso es duro decirlo

presupuesto fuera más alto pero tenemos que contar con lo que tenemos en ayudas a la conciliación

que no es derecho subjetivo la renta estandarizada afecta generando un umbral por debajo del cual las cuantías son iguales a las actuales

pero se amplían las situaciones subvencionables desde los ocho hasta los doce años

las ayudas a familia por hijos e hijas en la actualidad se entregan hasta cumplir siete años una ayuda por nacimiento

a familias por hijos e hijas que es derecho subjetivo la modificación afecta

en primer lugar en la actualidad por el primer hijo e hija se reciben entre cuatrocientos y novecientos euros en función de la renta aquí se aplica un criterio de reparto más justo pero a partir de aquí no por el segundo hijo o hija son mil cien por nacimiento y cuatrocientos euros al cumplir el año independientemente de la renta por el tercero y siguientes cinco anualidades de mil cien euros y dos de cuatrocientos en total durante los seis años de vida del menor seis mil trescientos euros el nuevo decreto

presentaremos la semana que viene prevé por el primer hijo igual que ahora entre cuatrocientos y novecientos euros en función de rentas por el segundo hijo por debajo de veinte mil euros de renta familiar estandarizada que no es lo mismo que la base imponible

renta novecientos euros al nacimiento y novecientos al cumplir el año es decir trescientos euros más ya sé que no es mucho pero para algunos

y quinientos al cumplir el año es decir quinientos euros menos para quienes tienen una renta estandarizada de más de treinta mil y podremos explicar

cuatrocientos euros al nacimiento y cuatrocientos euros al cumplir el año es decir setecientos euros menos por el tercer hijo y siguientes por debajo de veinte mil euros de renta estandarizada novecientos euros anuales todos los años

durante los primeros seis años de vida del menor es la misma cantidad que en la actualidad entre veinte mil y treinta mil euros quinientos euros anuales seiscientos euros menos

es decir setecientos euros menos en resumen siendo el esfuerzo del departamento igual o similar al actual se favorece más al segundo hijo y a la rentas más bajas frente a las rentas más altas

tanto por hacer que tengamos más hijos que no estaría nada mal sino sencillamente para combatir cuestiones tan fundamentales como es

yo señor consejero sigo sin entender cuál es el motivo de este cambio de criterio pero sí que creo que lo primero que me gustaría es

a la renta de estandarización porque aquí se está haciendo un uso muy particular de este concepto

se utilizaba para evitar la discriminación que suponía sobre todo en las familias numerosas

se utilizara una renta en la que no salía o no se reflejaba el hecho de que una familia tuviera uno tres o cinco hijos para eso

pero no para recortar las ayudas es que según lo que yo le he podido entender ahora utilizan este concepto para recortar estas ayudas

es a la pobreza infantil o sea desde su departamento utilizan la ley de apoyo a la familia para hacer frente a la pobreza infantil

no cree que ahí se podía encontrar mejor esas bolsas de pobreza a la que usted hacía referencia es que yo todavía no le he escuchado consejero

datos argumentos

nos hagan entender por qué toman esta decisión más allá de lo que yo le decía de un asunto presupuestario de que los números no le dan

de la misma manera que se ha hecho hasta ahora que no se hacía

no era un derecho recogido en una ley y las leyes están para cumplirse y si no se va a cumplir en esos términos porque se considera que tiene que ser de otra manera lo más

honesto y responsable sería venir a este parlamento y cambiar esa ley porque ese discurso suyo hace quince años que yo lo escuchaba en este parlamento

han evolucionado consejero esto de que todas las políticas de un gobierno están dirigidas a apoyar a la familia claro que sí que son trasversales claro que sí

se aprobó para ir un paso más allá porque lo moderno en este momento es precisamente por dónde se están fijando todas las políticas de apoyo a la familia que son las que se están estableciendo en europa que era por lo que aquí se debatía sobre las políticas apoyo de la familia y por eso se aprobó la ley en dos mil ocho

retrotraernos a debates de hace quince años y usted me dice que a ver si me creo yo que por las ayudas que me dé el gobierno vasco hay familias que se están planteando tener un hijo más

todas quite las ayudas es que no entiendo no nos da todavía datos de primero ha cambiado la situación en euskadi tenemos unos mejores índices de natalidad no bien necesitamos ese segundo ese tercer hijo sí

que reflexiones están haciendo pero no le parece que sería mas honesto que antes de tomar esa decisión de recortar esperaran a esa reflexión

a lo que consideren que es la nueva política de familia del gobierno vasco y entonces tomen las decisiones es que no me puedo creer

por un tema economicista de presupuesto cuando ustedes saben que tienen otras partidas y otras materias en las que verdaderamente podrían recortar y que en algo tan importante porque lo vuelvo a repetir no es un problema ideológico es un problema de país es un problema estructural qué estamos construyendo

y yo sinceramente no los veo con una política de apoyo a la familia les veo intentando escurrir el bulto en una situación de insuficiencia financiera en lo que efectivamente

y que han ido a lo más fácil pero han ido a lo más fácil

en la que más nos jugamos en euskadi y creo consejero que este gobierno debería replantearse esa decisión de modificar

un presupuesto aprobado redistribuimos

de los que tienen menos rentas y no renunciamos a lo que usted nos pide de hacer una auténtica política

y la tenemos que hacer juntos con independencia de que lo tenemos que liderar desde el gobierno pero usted señora quiroga y otros medios en las últimas semanas

no voy a explicar qué entiendo yo por rentas altas medias y bajas

el concepto de renta estandarizada no son los ingresos familiares es un indicador que además de esos ingresos tiene en cuenta otros factores como los miembros de la unidad familiar

y dos hijos o hijas sin discapacidad u otras circunstancias equivale a unos ingresos familiares de cuarenta y dos mil euros o cuarenta y siete mil en caso de trabajadores por cuenta ajena

no son veinte mil son cuarenta y cinco mil o cuarenta y dos mil y cuarenta y siete mil

de sesenta y tres mil o sesenta y ocho mil euros en función de si son o no trabajadores por cuenta ajena estamos hablando de otro nivel de rentas

por tanto son las rentas que recibirán menos de lo que reciben actualmente

las rentas que percibirán menos perdón de los que reciben actualmente son las que están por encima de cuarenta y dos mil cuarenta y ocho mil

todos los demás salen beneficiados el conjunto de la ciudadanía la mayoría de los ciudadanos vascos salen beneficiados

ha calculado que el cincuenta y cinco por ciento de las ayudas por primer hijo el que actualmente ya está sujeto a rentas cobrarían el máximo estarían en una situación similar igual a la actual en el caso del segundo hijo más del sesenta y cinco por ciento

a lo que cobran actualmente y en el caso de los terceros hijos hijas y siguientes algo más del setenta y cinco por ciento de nuestras familias cobrará el máximo de lo que contemple el actual decreto lo que hacemos está previsto en la ley

implantamos un sistema de reparto que nos parece con toda la

prudencia que haya que hacer sobre estas cuestiones que además pueda ser discutible pero que tenemos obligación de tomar decisiones la tenemos como gobierno

recojo sus críticas pero nos toca a nosotros desarrollar los decretos y lo hacemos con toda la bondad que podemos hacerlo

en detrimento de quienes más recursos tienen y ojalá venga pronto a este parlamento un auténtico debate sobre las políticas

barrio jauna zurea da hitza buenos días gracias presidenta lehendakari miembros del gobierno buenos días

el lehendakari iñigo urkullu y la asociación de familiares de presos de eta etxerat compartieron mesa diagnóstico sobre la necesidad de acabar con la política de dispersión un reto común sobre lo que trabajarán en los próximos meses la nota del gobierno hablaba que desde el gobierno se refirieron a posibles ámbitos de trabajo que profundicen

sorprendente todo indica que por parte del gobierno no hubo exigencia a los familiares de los etarras de que procediesen a la disolución de la banda y colaborasen con la justicia en el esclarecimiento de los crímenes sin resolver condena de los crímenes de eta

solicitamos al señor lehendakari respuesta a la siguiente pregunta en qué ámbitos va a trabajar el gobierno vasco con la asociación de familiares de presos y presas de eta etxerat

posibles ámbitos de trabajo cuáles son criticar al gobierno de españa criticar a instituciones penitenciarias
qué comparte usted con etxerat señor lehendakari muchas gracias eskerrik asko

solicitó una entrevista para presentar su balance del año dos mil catorce

reunión se centró en la problemática humanitaria que la política penitenciaria de alejamiento provoca a los familiares personas que no han cometido ningún delito los familiares el alejamiento de los presos produce un sufrimiento injusto e innecesario a las familias que además no se corresponden ni con el espíritu

de la ley hace usted referencia a la reunión

y el marco de relación propuesto por el gobierno vasco y yo distingo y distinguimos perfectamente en el gobierno la naturaleza de quiénes son nuestros interlocutores

de la reunión que sea sea pública o sea privada y el marco de relación insisto propuesto por el gobierno vasco se contiene en las iniciativas del plan de paz y convivencia y más en concreto

que entregamos y pusimos a su disposición en la reunión así como también los encuentros entre víctimas y víctimas y entre víctimas y victimarios mire yo comparto las palabras de mandela que en su contexto

yo resumiría en decir el arma más potente es hablar con la gente

y solamente se puede lograr si somos capaces de acercarnos

de entendernos esta es la responsabilidad de un gobierno y es el deber de un gobernante eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

de presos de eta no era para deslegitimar la violencia y el terrorismo de eta precisamente mire

sigue justificando la andadura de eta usted dos cosas positivas entiende su sufrimiento y critica la dispersión penitenciaria

para mí dos negativas no pidió a esas personas que promoviesen la disolución de eta no pidió la condena de los crímenes

su secretaría es un puro retroceso político todo gira alrededor de lo mismo todo para que usted y el señor fernández hagan oposición

sus partidas presupuestarias su connivencia

y la orientación diga secretaría de presos y conflictos esa es su hoja de ruta convivencia no su propia conveniencia y la convivencia política con el mundo de la izquierda abertzale la suya esa es la que usted quiere

en esas claves políticas que el pnv y bildu hoy comparten hoy pactan en esta cámara esa es la convivencia esa es la conveniencia suya señor lehendakari nuestra conveniencia nuestra convivencia no puede ser la de jonan fernández y la de la etb

y la equidistancia usted hablaba antes de transferencias pendientes la suya debía ser la de la ilusión y la convivencia y no la de la cesión

permanente y las víctimas señor lehendakari no se ha reunido con ellas

lehendakari mire el otro día las víctimas catalanas decían que estaban indignadas por la recepción de urkullu a etxerat lo hacían en público y es verdad

hablaban de ese estupor que les causaba su actitud en relación con estas cuestiones señor lehendakari

qué tiene que aportar a la convivencia díez usabiaga con el que su secretario de desmemoria se reúne es decir su secretaría de paz y convivencia va de presos de eta señor lehendakari no tenía que ir de deslegitimar precisamente a eta muchas gracias

señor barrio se ha leído usted de verdad el plan de paz y convivencia se ha leído usted de verdad el plan hitzeman se ha leído usted de verdad

del plan de paz y convivencia cada una de las dieciocho iniciativas mire diez de diciembre del año pasado declaración universal de los derechos humanos

del diálogo entre víctimas y víctimas asistió el partido popular ustedes anuncian el día veinticuatro de marzo

para poner la placa o la primera placa o la primera piedra del centro memorial de las víctimas participa el gobierno vasco en el centro memorial de las víctimas

a qué nos dedicamos a qué se dedica la secretaría general de paz y convivencia

mire el gobierno de santos trabaja por el proceso de paz

señor barrio es bueno para colombia y para el mundo entero voy a dar apoyo político y ayuda en todo lo que se me pida en cualquier organización internacional fin de la cita sabe a quien corresponde la cita sí lo sabe usted perfectamente lo ha adivinado ni más ni menos que al presidente español señor mariano rajoy

ahora para euskadi ni interlocución ni apoyo ni ayuda una irresponsabilidad incomprensible señor barrio begira

andrea lehendakaria sailburuak bueno está claro que este gobierno está primando criterios

así varias resoluciones recientes de los tribunales de justicia lo atestiguan la sentencia del juzgado contencioso administrativo número seis de bilbao

el tribunal contencioso administrativo de vitoria habla claramente de abuso de poder cuando no se nombró al aspirante

está claro que se están vulnerando los principios inherentes a un proceso de selección por eso le preguntamos señor lehendakari

pregunta usted sería conveniente que la hubiera respondido usted pero me imagino que será el consejero de sanidad entonces el que la responda y le preguntamos si va a seguir primando requisitos partidistas en la selección de puestos de osakidetza

desde el departamento de salud que no de sanidad para los concursos de provisión

como es normal cuando cualquier aspirante entiende que no se cumplen los principios por los que deban regirse es lícito recurrir

esto quiere decir señora garrido que en el caso de las jefaturas que ha mencionado como en cualquier otras de las que se han producido esta legislatura y las anteriores los sistemas de provisión funcionan y están dotados de todas las garantías legales inherentes a cualquier proceso de selección en la administración pública osakidetzako erdi mailako

baina galderaren zioan diozun erdia oker dago quiero entender que las incorrecciones que ha plasmado en la justificación de la pregunta

se deben a la precipitación y no son intencionadas el exconsejero de sanidad al que usted se ha referido es en la actualidad un médico de la osi

cruces un profesional muy capacitado como reconocen sus compañeros

y honesto señora garrido que no ha sido nombrado jefe de servicio de medicina interna sino que como resultado de un concurso fue nombrado jefe de sección

sujeto a los principios de publicidad igualdad capacidad

huelga decir que una jefatura de sección no es ningún cargo es un mando intermedio en este caso

universitario de cruces exactamente una de las ciento cincuenta y uno jefaturas de servicio y sección de las que el hospital

hay tres jefaturas de sección todas ellas en la dependencia

a esta pregunta porque no sabemos si son casos aislados si son dos resoluciones judiciales recientes digo que nos hubiera gustado que nos hubiera respondido el lehendakari por esode

de resoluciones judiciales que apuntan en esta dirección en la dirección de que se priman

la pregunta está claro que se han cometido irregularidades injerencias en ambos procesos de selección en el caso del nombramiento

si leemos la sentencia imagino que usted también la habrá leído claramente de irregularidades en la composición del tribunal en los criterios de baremación de los méritos en la motivación insuficiente

declarando no ajustada a derecho la adjudicación y diciendo claramente que se han vulnerado los principios de transparencia y publicidad eso es lo que dice la sentencia

en el caso de la jefa de servicio de dermatología del hospital universitario de álava está claro que se ha manipulado un proceso de selección con el objetivo

la sentencia aquí es meridianamente clara habla de abuso de poder y dice claramente y de forma contundente lo que se sabe es que lo que realmente se pretendía era no finalizar el proceso

mayor puntuación los mejores méritos ustedes

obtenido mayor puntuación la sentencia habla claramente de abuso de poder concluimos por lo tanto diciendo que estamos ante claras intromisiones en los procesos de selección detrás de las cuales se están escondiendo intereses políticos y se han antepuesto porque hay que decirlo claramente porque se ve en estos procesos de selección en estos nombramientos concretos

que se han antepuesto intereses personales y criterios políticos a la capacidad y profesionalidad nosotros no dudamos de la profesionalidad del señor inclán

a la persona que por derecho le corresponde porque ha obtenido los mayores méritos y la mayor puntuación y parece que en estos casos según las resoluciones judiciales que tenemos en este momento

no se pueden volver a repetir y pedimos una rectificación y reparación claramente de las injusticias que se han cometido porque está claro que injusticias se han cometido

pues entonces habrá comprendido perfectamente que son contradictorias y que los criterios de selección del tribunal de la medicina interna si se hubiera aplicado a los de dermatología

que las dos están en fase de recurso por lo tanto ninguna de las dos es firme mire el pasado cinco de marzo el tribunal responsable de la sección

ya hizo público que había solicitado el recurso de la sentencia sentencia

reconoce únicamente errores de procedimiento administrativo

la sentencia en cuestión advierte que únicamente no había ningún miembro del ivap que tampoco había en la de dermatología y sin embargo

y por otro lado como haremos constar en el recurso nunca han participado en los tribunales

mire decir lo que usted ha dicho revela una importante falta o de rigor o un claro desconocimiento de los procedimientos para nombrar jefaturas

mire en esta legislatura se han celebrado sesenta y cuatro concursos como este sesenta y cuatro

señorías alguien podría pedir benevolencia para el portavoz de un gobierno al que se le acumulan los problemas cuando alguien tiene que ser portavoz

sobre todo desde esta bancada alguien pediría esa benevolencia pero bueno todos tenemos nuestro corazoncito es decir

kutxabank recortes problema en e i te be

alguien podría pedir benevolencia para un portavoz que tiene que afrontar semejantes problemas cada vez que comparece y alguien podría fruto de esa benevolencia también decir bueno este portavoz cada vez que sale

y meter el dedo en el ojo para crear conflictos con otras administraciones o con otros gobiernos para desviar la atención

al ejecutivo al gobierno de españa por qué es usted permanentemente más portavoz parlamentario de la oposición que portavoz de un gobierno

permanentemente la confrontación por qué ahora con la ejecución de una resolución judicial que encarcela a un terrorista por los delitos cometidos en españa por los graves delitos cometidos en españa por dar cuenta a la justicia

no cree usted que tenemos que superar también esa dialéctica y esa forma de relacionarnos entre nosotros

no es lo mismo cuestionar el estado de derecho que hacer críticas a todo aquello que impide su correcto funcionamiento

del estado democrático en su batalla contra el autoritarismo del antiguo régimen sin embargo

a poner de manifiesto y a criticar si hace falta aquellas todas actitudes aquellas conductas

que perturban la independencia judicial o que vulneran derechos fundamentales y principios generales

en este comienzo de año en esta tarea en este compromiso de denunciar todo aquello que redunda en perjuicio de lo que mal funcione en el estado de derecho

en muy pocas semanas tres magistrados de la sección primera de la audiencia nacional y trece

del tribunal supremo la sala de lo penal del tribunal supremo han pedido amparo al consejo general del poder judicial

provocadas por declaraciones de miembros del gobierno que han considerado que perturbaban su independencia las mismas a las que hice referencia yo tomando como motivo y

precisamente las propias declaraciones de los propios jueces no es lo que diga erkoreka ni este portavoz de gobierno es lo que están diciendo los propios jueces algo inédito que no tiene precedentes tres magistrados de la sección primera de la audiencia nacional y trece de los dieciocho miembros

se dijeron cosas importantes a usted le parecerá irrelevante pero nada menos que un ministro

llega a decir si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible de delito de prevaricación

inmediatamente después un alto cargo institucional del partido popular dice hay una sección de la audiencia nacional que está a favor de aplicar una doctrina judicial que siempre es favorable a los terroristas eso lo dicen

miembros del gobierno de su majestad que un portavoz humilde de gobierno autonómico se haga eco de la queja de los jueces y de los magistrados por estas injerencias y exprese su preocupación por la incidencia negativa que se está planteando esto en el estado de derecho es lo mínimo que se puede hacer

señor erkoreka mi apellido es sémper y lo va a seguir siendo entiendo que

intervención inicial se debe a la falta de argumentos

la grosería debería de ser algo superado mire

sobre los hechos políticos judiciales que suceden en la sociedad en la que tienen que intervenir eso entra y pertenece al ámbito de la discrecionalidad y de la libertad política de unos y otros gobiernos a la hora de manifestarse anda que su gobierno se ha manifestado también sobre sentencias judiciales en muchas ocasiones

permanente del normal funcionamiento de las instituciones democráticas del estado de derecho las presiones se suceden claro que sí ustedes intentan presionar

las investigaciones por ejemplo en relación con los contratos de publicidad que el gobierno vasco había adjudicado por ejemplo

de presionar a jueces lo que no puede ser

posición razonable de un gobierno que se pretende sensato es que solo sea noticia por la bronca

al adversario o a otro gobierno no pueden estar ustedes a dios rogando

no puede ser que pretendan buscar el entendimiento y el acuerdo y la respuesta positiva como el lehendakari apelaba

y además injustificadamente poniéndose en la tesis más antisistema

y otros días para ser muy prosistema cuando el lehendakari comparece

no pueden estar ustedes tensionando la normal relación que debiera de haber entre gobiernos con discrepancias porque la política es y la democracia es también discrepancia y confrontación

por ser no el portavoz de un gobierno sino el portavoz más mamporrero de un grupo parlamentario

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor sémper me acusa usted de ser

le voy a reproducir frases pronunciadas en relación con ese mismo episodio por otros distinguidos responsables de la administración de justicia

el presidente del tribunal superior de justicia del país vasco decía que

en ese momento se organiza una gran presión contraria a la independencia judicial porque intervienen

miembros destacados del gobierno auténticos ministros

encabezándolo donde dice carece de una justificación mínimamente razonable y solo un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales

del mismo tenor no de políticos no de portavoces gubernamentales de los propios jueces y magistrados que se quejan de las intermisiones del gobierno solo me hago eco de ellas solamente

está para ganar dinero pero no solo para eso ni euskaltel ni ninguna de las empresas de este país están solo para eso tienen un compromiso con este país un compromiso con el empleo

si no evidentemente no estarían aquí probablemente estarían ganando mucho más dinero en otro sitio y eso es prueba de su compromiso y si euskaltel ha hecho algo durante veinte años y

es mantener empleo conseguir crecer tener buenos resultados mantener

hacerlo crecer tener más inversiones tecnológicas y eso es lo que se está buscando también con la salida a bolsa garantizando la permanencia en euskadi porque eso está en el pacto de socios

a finales de enero las empresas y los centros tecnológicos seguían sin conocer

correspondiente el ejercicio del dos mil catorce lo que desalienta y perjudica

el asunto es más grave porque el año pasado hicieron ustedes lo mismo en enero de dos mil catorce tuve que preguntarle sobre el retraso en la concesión de las ayudas correspondientes a dos mil trece usted reconoció el retraso pero no comunicó la resolución a ninguna empresa a tiempo

en marzo el primer pago y este año la misma tónica ha enviado usted las resoluciones por esos mismos programas entre el tres y el nueve de febrero

es cierto que por petición ha aumentado usted el plazo de la solicitud para gaitek en ocho días pero esto es un mínimo alivio puntual porque en estas fechas se juntan para las empresas varias obligaciones que les exigen

una gran dedicación en poco tiempo y no todas pueden dar respuesta especialmente las pymes que son la mayoría la cuestión es por qué no lo solucionan si es un asunto recurrente

tienen que hacer el cierre del ejercicio pasado también tiene que hacer la justificación de la subvención del dos mil catorce de la que se acaban de enterar en febrero si la tienen

la que les da usted cada vez menos tiempo y eso además este año se lo han comunicado más tarde es decir menos tiempo para las empresas y más tiempo para la gestión de la administración y todo

más tarde ese es el hecho además las pymes tienen también que armar la nueva solicitud de subvención lo que lleva tiempo y personas porque en algunas convocatorias

el incumplimiento de los objetivos europeos en estas convocatorias usan fondos europeos destinados a incentivar

que la investigación debe iniciarse una vez que se haya concedido la subvención y usted comunica la concesión dos meses después de acabado el año en el que habría que haberlo hecho esto es un dislate así que dígame por favor consejera no cree usted necesario revisar los plazos

eskerrik asko presidente andrea sí señor reyes somos conscientes de las dificultades de los retrasos en la adjudicación y en la notificación

en julio de dos mil catorce hemos tenido que adaptar nuestros programas a ese nuevo marco comunitario

dos mil veinte ha sido aprobado en diciembre de dos mil catorce y por tanto todas esas nuevas convocatorias

y además la orden es de once de febrero de dos mil quince sin embargo sí

dice que para garantizar el efecto incentivador podrán acogerse a los mismos los proyectos que se inicie con posterioridad a la fecha de presentación de solicitudes no de adjudicación

por tanto dado que el marco europeo se había retrasado y nuestros programas también han recibido el beneplácito de la comunidad más tarde por tanto nos hemos retrasado dos meses en la puesta en marcha del programa las empresas tienen menos tiempo para presentarlo y somos conscientes de que este año hemos dejado únicamente un mes para que puedan presentar los proyectos somos conscientes de la dificultad hemos tratado de ampliar un poquito el plazo

pero a partir de ahora además tienen que empezar a trabajar ese proyecto para que después pueda ser compatibilizado y computado dentro de este programa de ayudas usted conoce además que este año hemos modificado

de tal manera que la justificación de esos proyectos sea mucho más sencilla a partir del próximo año porque también en la justificación y en el cómputo de las ayudas había dificultades

venían a revisarlo más la revisión que se hacía desde el propio gobierno por tanto hemos tratado de modificar esa situación y de paliar los problemas que somos conscientes que estamos causando pero este año cierto es que no hemos podido hacerlo de otra manera eskerrik asko

sí consejera la cuestión es que no es culpa del consejo de europa porque qué pasó

la convocatoria no tenía ninguna influencia externa y como contestó usted a finales de febrero es decir

en el que tenía que haberse ejecutado además es una mala gestión evidentemente porque es recurrente y no tiene otra cuestión por eso

hay que modificarla hay que mejorarla y yo le propongo

que haga caso de europa en todos los aspectos no solo para la justificación de las empresas para que tenga un mayor detalle en la justificación sino en la actuación de la administración en las buenas prácticas de la administración porque no coge los elementos

es decir por qué no lleva el camino rápido en el que divide en varios periodos europa es lo que propone

y entonces aparte de permitir que hagan un trabajo más pausado

más camino más facilidad para resolver el asunto es que este gobierno lo que tiene que aplicarse en todos los aspectos es

porque en este caso está perjudicando a las personas que se dedican a este asunto cómo van a presentar

unos retrasos que no deberían ocurrir este año hemos modificado la convocatoria y por supuesto hemos tratado de que esa justificación sea más sencilla más dificultad en la presentación sí pero después más facilidad en la justificación pero en cualquier caso anoto

para posibles nuevas modificaciones del programa y que seamos más eficientes y las empresas desde luego reciban la comunicación lo más rápidamente posible y no solo la comunicación sino que seamos capaces de que ese dinero y esa

ya sabemos que en otros lugares la tasa de pobreza es más alta pero aquí la desigualdad es mayor las diferencias son mayores y los pobres son cada vez más pobres por diferentes motivos en ocasiones los posibles perceptores de renta de garantía de ingresos o las aes no acceden al sistema

porque no cumplen los requisitos porque desconocen que optan a esos derechos o porque por un motivo o por otro

también conviene recordar que no cabe duda de que durante los últimos meses los derechos sociales y los servicios públicos que los prestan se han visto afectados por polémicas injustas

y eso sin duda también evita que haya personas o familias que no reclamen los derechos que por ley les corresponden lo preocupante es que bien por un motivo o por otro hoy en día entre nosotros y nosotras existen personas que se encuentran en una situación de desprotección

una cuarta parte de las personas en riesgo de pobreza no accede a la renta de garantía de ingresos eta talde horretan langabezian daudenak bereziki kezkatzen gaitu

jarri behar ditugu gure ahalegin nagusiak kolektibo horiek baztertuta ez geratzeko tenemos que luchar contra la cronificación del desempleo una situación que deriva en cronificación de la pobreza en definitiva a una situación de exclusión social severa señor toña si solo cuatro de cada diez parados y paradas vascas recibe una prestación contributiva

en qué situación se quedan los demás qué pasa con las personas las familias que no cuentan con ningún tipo de ingreso de qué viven

gracias a entidades del tercer sector y por eso estamos convencidas de que tenemos que reforzar nuestro sistema tenemos que poner más recursos los que sean necesarios para que todas las personas que vivimos en araba

lo hagamos con un mínimo de dignidad eta guk argi dugu

el programa de los cuatrocientos veintiséis euros

euskaraz y tenemos muy claro que ante esta situación no bastan medidas

ni puntuales hay que tomar medidas mucho más globales que mejoren la situación de exclusión social que están padeciendo tantas y tantas personas en el pleno monográfico del pasado mes de noviembre sobre pobreza y empleo

instando al gobierno a integral en el sistema de protección social

como por ejemplo los que se han quedado sin prestaciones por desempleo

que el aumento de la desigualdad es una cuestión crucial y nuclear en nuestra sociedad el aumento

el parlamento nos insta a tomar las medidas necesarias para fortalecer nuestro sistema de protección social que constituye

de álava bizkaia y gipuzkoa que se encuentran sin cobertura de desempleo y comparto con usted también el drama que supone el desempleo

no podemos hacer todo pero hacemos todo lo que podemos lo creemos

pero no solo para que los y las trabajadoras que por circunstancias de la crisis pierden su cobertura de desempleo sino para el conjunto de las personas que se encuentran en situaciones

ha dicho usted señora blanco que son las entidades del tercer sector las que muchas veces les ayudan yo tengo la obligación de recordar que a ese tercer sector desde nuestro departamento desde las políticas sociales se le ayuda precisamente para que preste esas ayudas puede que nuestro sistema no sea aún el que todos deseamos seguro

puede que no se hayan consolidado todos los derechos que a todos nos gustaría y desdeluego es evidente

de todo el dinero que nos gustaría invertir en políticas de empleo de vivienda y de servicios sociales pero es que de eso también tenemos que ser conscientes

todo tiene que salir de un mismo fondo y de unos recursos siempre escasos y el principio principal de la política es precisamente el principio

eficiente y equitativa de recursos siempre escasos pero tenemos que empezar por reconocer lo que tenemos que no es poco

hacerlo más justo y efectivo pero ya que la interpelación es muy concreta y relativa al ámbito del empleo y el acuerdo alcanzado

que solo dos días antes en consejo de gobierno nosotros decidimos recurrir al tribunal constitucional la ayuda de cuatrocientos veintiséis euros a personas en paro con cargas familiares

nosotros entendemos que estas ayudas deben financiarse de acuerdo con el sistema de concierto económico y sabe señora blanco que

si se nos hiciese caso de nuestra legítima pretensión setenta y cinco millónes de euros más para nuestro presupuesto pero no nos lo han dejado

a pesar de nuestro requerimientos para negociar este incentivo de fomento del empleo el gobierno español ha vulnerado la competencia

transferida el año dos mil diez y esta ayuda es parte del programa de activación para el empleo pactado en diciembre entre el gobierno español

pero a nuestro juicio vulnera competencias en materia de políticas activas de empleo así como la relación financiera que hemos establecido entre euskadi y el estado a través del concierto económico

esta ayuda de acompañamiento no tiene naturaleza de una prestación por desempleo o de otro tipo de prestación de la seguridad social sino que es un incentivo de fomento del empleo que se incluye en el ámbito materia de la competencia transferida por ello

al respecto y financiarse de acuerdo al sistema de concierto económico y no tal y como lo ha hecho el estado por otra parte tampoco compartimos que la ayuda se haya hecho incompatible con otro tipo de prestaciones como es el de la rgi porque evidentemente esto supone que todos los ciudadanos vascos van a optar por la rgi que es bastante mejor que la ayuda

el estado lo más lógico es que estas personas perciban la ayuda extraordinaria que ha puesto el estado y que a partir de ahí si cumplen los requisitos previstos por nuestra legislación

hasta alcanzar las cuantías establecidas lo cual por otro lado nos permitiría disponer otra vez

algunas de las cuestiones que queremos atender todos y en este mismo ámbito del empleo como sabe está en vigor el plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis con sus éxitos y sus fracasos este ha sido objeto de negociación también

este mismo mes en lanbide y en el consejo de gobierno acuerdos en materia de empleo joven parados de larga duración acreditación de competencias de personas afectadas

planes locales de empleo para mayores de cincuenta y cinco años ya sé que a veces son un parche ya los sé que no es todo lo que queremos pero es lo que podemos todas ellas en beneficio de las personas que demandan empleo y no lo encuentran tenemos solicitada la comparecencia en comisión de empleo y política sociales y viviendas para explicar nuestro plan de actuaciones en el año dos mil quince

como se hizo ya el año pasado recordaran que el balance recogía con una incidencia directa en el apoyo a la generación cerca de diez mil seiscientos empleos y más de cuarenta y cuatro mil personas en términos de mantenimiento de empleo

no soy muy partidario de cifras sobre todo si lo que hacen es decir lo bien que hacemos las cosas

y en breve esperamos además renovar las convocatorias y promoción de empleo

nuestra primera actuación en la protección de estas personas es incidir en el desarrollo del programa de inversiones del programa marco por el empleo y la reactivación económica ya sé que suena muy bien y a veces se nos llena la boca la segunda

y la tercera el fortalecimiento de nuestro sistema de protección social son los instrumentos que tenemos en nuestra mano y son los instrumentos que utilizaremos para potenciar nuestro empleo